señor maneiro yo he empezado mi intervención con el reconocimiento

al que he hecho referencia porque suponía que efectivamente uno de los objetivos que usted perseguía con la presentación de esta interpelación era reivindicar para sí la paternidad de ese debate la primogenitura de ese debate cuando otras formaciones políticas han irrumpido en el escenario político haciendo planteamientos también que inciden

cuando quienes plantean estas cuestiones ahora en esas ruedas de prensa a las que ha hecho referencia usted no estaban en estas posiciones me parece bien

reivindica lo que considera que tiene que reivindicar y usted lo hace

en fin en la tribuna y en la cámara que es donde hay que hacerla

este planteamiento mayoritario de la cámara puede cambiar pero yo lo que le he dicho en nombre del gobierno es que en un régimen parlamentario

pero en un régimen parlamentario cuando el parlamento dice párese

que voy a constituir un grupo de trabajo para que estudie este asunto el gobierno lo que tiene que hacer es

elabora los informes que le pide el parlamento y comparece y todo esto lo hemos hecho que esto lo vaya a cambiar bueno pues si cambia el gobierno actuará en consonancia con lo que determine las mayorías de la cámara

no creo que en ese sentido se vaya a producir un cambio

se concluiría el trabajo que la cámara se ha dado a sí misma la cámara hace ya dos años dijo que iba a constituir un grupo de trabajo para que

la ponencia desarrolla su trabajo aprueba formalmente sus conclusiones y por tanto no ha cambiado de criterios que sencillamente ha cumplido la labor que se había dado a sí misma

la posición del gobierno y la posición de este consejero en ningún momento ha sido la de sacralizar ninguna norma jurídica de entre las que integran el ordenamiento jurídico

no solamente es como cualquier otra ley ordinaria reformable basta con mirar su

a las susceptibilidad de las reformas que no están presentes en otras normas y que por tanto

en que el esquema del reparto competencial que se contemplaba en su articulado era susceptible de reformas esto no es habitual

su condición de norma modificable pero es que además

a veces a iniciativas de la cámara con proposiciones de ley salidas de la cámara y a veces

la formación política que considera que es una norma sagrada no susceptible de modificación

de planteamientos sagrados nada con respecto a mi posición en ningún momento he dicho yo ni en el pasado ni tampoco en esta tribuna en el día de hoy que considere que la lth no a de ser modificada la posición del gobierno está recogida

y que yo defendí en la ponencia en la que está usted también mantuvimos una interesante conversación un interesante intercambio de opiniones en relación con la arquitectura institucional y en relación ojo

jurídicos idóneos para abordar cada una de las modificaciones que se plantean antes he hecho referencia aquí el icono de la lth solo resolvería una parte mínima de los problemas que identifica usted en la arquitectura institucional vasca para reformar las cuestiones que usted considera que necesitan reforma haría falta reformar modificar el estatuto

con la lth poco tendríamos en relación con los cuatro parlamentos

en cualquier caso yo en nombre del gobierno solo puedo insistir una vez más en que en este asunto está a disposición de la cámara

cuando concluya la hoja de ruta que se ha marcado a sí misma cuando concluya sus labores y apruebe las conclusiones de la ponencia

que han tenido lugar en el seno de ese grupo de trabajo eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa daniel maeztu perez

hori bai dakigu eta hau renferen datuak dira movilidad y demanda de la línea de alta velocidad y vasca bi mila hamaika egindako txosten batean

bilbo gasteiz y donostia sería más rentable que el tav eso no lo dice dani maeztu esto lo dice un catedrático de economía aplicada

es simplemente la lógica conclusión de hacer un riguroso análisis coste beneficio no de contratar ad hoc informe sobre supuesta repercusiones económicas directas de una inversión pública

no no un informe coste beneficio riguroso es una conclusión lógica que deriva del análisis internacional de la realidad de la alta velocidad por lo tanto señor lehendakari señora oregi o ambos

un revisionismo continuo del tav como dijo ayer la señora oregi no

y dónde se fundamentan esos datos si como sociedad vamos a hacer un sacrificio económico ingente social y medioambiental también

el tren de alta velocidad a las empresas constructoras en estos momentos ya sabemos los beneficios que les está repercutiendo queremos saber al conjunto de la sociedad

económico y social cuáles son los beneficios que le va a reportar y sobre todo
en qué datos e informes se basan esos supuestos beneficios eskerrik asko

donostia gasteiz treinta y ocho eta bilbo gasteiz veintiocho euskal y aren lan guztiak

atendiendo al cuerpo de su interpelación había preparado sobre todo una cuestión de tiempos porque era lo que usted me

pero en cualquier caso voy a retomar el punto de mi primera intervención hoy en esta cámara ligado al cambio climático el cambio climático

los científicos para la comunidad científica internacional es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos y todos los gobiernos sean estatales regionales estamos empeñados en hacerle frente porque como he dicho

no tenemos un plan b porque no tenemos un planeta b y para poder atacar a ese problema debemos de hacerlo atacando a los sectores que son

causantes de esos gases de efecto invernadero y de esa problemática hete aquí que uno de los problemas más importantes o uno de los sectores causantes de ese cambio climático

específico del país vasco de euskadi el treinta y seis coma seis por ciento del total del consumo energético de nuestra comunidad se debe al sector del transporte pero es que además el veintiocho por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero son debidas al transporte de ese transporte si atiendo al reparto modal que tenemos en la comunidad autónoma me encuentro que el noventa y cinco por ciento de nuestro reparto modal

y además si pienso o si miro los datos que me dan el transporte de mercancías me encuentro que el ochenta por ciento está ligado a la carretera

sabemos que es el modo más ineficiente sabemos que tenemos que corregir eso desde luego yo estoy absolutamente convencida de que eso es imposible de corregir con unas líneas diseñadas para trenes de vapor en el siglo diecinueve eso lo tengo meridianamente claro

revise usted también un poco que propaganda lee voy a recurrir a la de ecologistas en acción la página web de ecologistas en acción

tienen un análisis muy interesante sobre el transporte y citan un libro también muy interesante de ediciones catarata

hacia la reconversión ecológica del transporte en españa ellos toman de referencia a españa pero bueno vamos a utilizarlo

que el automóvil es el medio menos eficiente con un consumo energético casi el doble de los medios ferroviarios casi cuatro veces más que el autobús además dice que el automóvil es un medio imposible de democratizar porque cuanto más se extiende es más ineficiente

me encantaría que hicieran un análisis del transporte en helicóptero les voy a pedir a estos de ecologistas en acción en cuanto a calidad del aire

dieciséis mil muertos prematuros por contaminación en españa dicen los estudios

sabe por qué causa fundamentalmente tráfico transporte transporte por carretera accidentalidad

accidentes para la proporción del número de personas que transporta ruido la manera más ruidosa de moverse es el coche consumo del territorio y del espacio público

estudios de costes hay que contarlo todo no vale solo contar unas cosas también en el consumo del espacio público

si utilizamos el medio ferroviario son nueve metros si utilizamos el autobús son treinta y cinco

en coche que en transporte público en definitiva mantener nuestro modelo actual el que teníamos

a colapso a ineficiencias a consumos del territorio nosotros tenemos un modelo alternativo que está insertado en las políticas europeas y en lo que están haciendo los países más avanzados de europa mire usted suiza noruega holanda reino unido

ahí estamos trabajando para cambiar esta realidad que no nos gusta cuál es su plan eskerrik asko oregi andrea

vienen ustedes los máximos responsables de las políticas de movilidad que se han hecho en este país los máximos responsables de haber llenado de cemento y de haber echo carreteras como la supersur en este país

ustedes que son los responsables del reparto modal que existe hoy en día en el transporte los que han dado prioridad al medio menos eficiente como es la carretera

quienes han dado prioridad a la carretera de qué vamos ez

onura sozialak benetan tamalgarria pero lo peor de todo esto es que lo saben ustedes esto no es un tren o un medio de transporte concebido con una finalidad social para conseguir una rentabilidad social no se concibió así y por lo tanto no va a ser así

está concebida como en su día se concebían las calzadas romanas para la expansión del imperio entonces el romano ahora el imperio de la globalización y el desarrollismo para eso se hizo con esa estrategia de seguir

nuestra tierra suponía rentabilidad económica y social y lo único que eso pone es

pero ninguna rentabilidad social posteriormente

bata da dot pagatuak directrices de ordenación del territorio

las tres están en marcha las tres se están definiendo se están trabajando con los diferentes agentes y las tres definen como una de las cuestiones fundamentales la cuestión de los transportes y dentro de los transportes esta línea la línea de alta velocidad porque nos va a permitir la línea altas prestaciones ya sabemos que en la cuestión de la velocidad

y definen que esa línea de altas prestaciones es nuclear y clave para cambiar el modo de funcionamiento y la movilidad de nuestro país

no solo aquí en todo nuestro entorno occidental vaya usted sino también a mirar bueno en europa desde luego si va a estados unidos pues más de lo mismo

de nuestro entorno europeo pues nos vamos a encontrar con que nosotros tenemos cuatrocientos treinta y cinco coma nueve turismos cada mil habitantes

eso es nuestro entorno no somos un capricho de la naturaleza porque tenemos carreteras es así en todo nuestro entorno

orientarnos hacía lo que va a ser nuestra sociedad en el futuro estamos haciendo una red para dentro una red que va a durar ciento cincuenta años como la que tenemos en este momento que viene del siglo diecinueve

tenemos que pensar en el envejecimiento de la población con un porcentaje altísimo superior a sesenta y cinco en pocos años que va a ser demandante de este tipo de transportes

legebiltzarkideok especialmente y después también antes pero digo especialmente después del auto del juzgado de instrucción número cuatro de vitoria gasteiz

por una presunta trama de corrupción en torno al número dos del pnv de álava

se han sucedido digo especialmente después numerosas declaraciones

de dirigentes políticos estamos hablando de un caso hay presuntos delitos que se están investigando ya se ha acabado la fase

se va a abrir el juicio oral y que se han podido cometer delitos como prevaricación cohecho tráfico de influencias blanqueo de capitales malversación de caudales públicos el objetivo de dicha trama era la obtención de contratos públicos en forma irregular y el cobro de comisiones

kanpoko komisioak kobratzea declaraciones como las

institucionales del partido nacionalista vasco pretenden claramente desprestigiar y presionar la actuación

instrucción al señalar que se había limitado a copiar el ochenta por ciento delas conclusiones aprobadas por la comisión de investigación del parlamento vasco

cuando sus decisiones está claro que no les gustan les molestan o les perjudican cuando se dice que detrás hay una intencionalidad política clara

ramos epailearen ekintzan cuando se dice que el auto del juez es un corta y pega una trascripción literal de las conclusiones de la comisión de investigación

se arremete digo contra la división de poderes y la independencia judicial

todas estas declaraciones como digo van en la misma línea

el pnv ha llegado también a insinuar que detrás de esta investigación hay un interesado impulso político que hay un prisma político que se le pudiera querer imprimir a este proceso en un año electoral a este proceso judicial

hablaba de la quiebra de las garantías procesales el propio lehendakari

lamentaba la judicialización de la política y la politización de la justicia

en un proceso preelectoral son cuestiones

y de declaraciones públicas que ha hecho usted lehendakari por lo tanto no veo cómo se puede extrañar

que por lo tanto vamos a ser respetuosos con el sistema de derechos y garantías y vamos a dejar que los procedimientos judiciales se tramiten con sus procedimientos establecidos eso sí luego añadió que cuando salga la sentencia habrá ocasión de hablar de ella luego también se permite dar lecciones el señor

en ese respeto institucional que acompaña a muchas de las declaraciones de este

en anunciador del contenido de las sentencias que van a dictar los jueces o cuando dice el propio señor erkoreka que siempre hay presiones a los jueces por el pp

judiciales la justicia desde luego hay que decir que no está al albur de los intereses y exigencias del partido nacionalista vasco

atacan y no de forma puntual sino de forma reiterada a quienes investigan tratan de esclarecer y llegar al fondo de asuntos sobre cuestionesi lícitas y presuntos delitos

obstaculizar algunos como ustedes se creen que los tentáculos del ebb tienen que llegar hasta los mismísimos tribunales pues mire

o quieran cambiar determinados principios a su conveniencia la independencia de los tribunales de justicia es precisamente la salvaguarda de nuestros derechos

ustedes atacan con todo este tipo de declaraciones al poder judicial sin escrúpulos cuando las resoluciones nos quieren enseñar la verdad

la imagen inmaculada que nos han querido vender a la sociedad vasca luego claro tratan de hacer su teoría extensiva como ayer hizo la señora

se quedó más ancha que larga cuando dice que compara el caso de miguel con los excesos de la justicia con el entorno de eta

siempre la justicia se extralimita en los temas en el monotema

acusó también porque no solo le toca al partido popular acusó al gobierno del señor zapatero de utilizar el tribunal constitucional como arma política a propósito de la consulta del señor ibarretxe

del magistrado marlaska de citar como imputado a un miembro a una ejecutiva nacional de un partido

con el señor ibarretxe del anterior gobierno del anterior decía que las actuaciones judiciales no pueden salir gratis

insinuaba que los presidentes el tribunal constitucional y del tribunal supremo

que era consejero de justicia

para todos para las instituciones para los partidos que gobernamos o que han gobernado a nivel nacional son el adn del funcionamiento del nacionalismo y especialmente

una vez constatado y finalizada

conocido el caso de miguel que desde luego evidencian claramente una concepción de país y de la democracia y desde luego le quiero decir que a algunos nos recuerda más a épocas ya pasadas o a prácticas desde luego de otros regímenes el consejo general del poder judicial ya dejó constancia de su preocupación

a raíz de diversas resoluciones importantes y pronunciamientos importantes del tribunal constitucional y del tribunal supremo y a algunos

el derecho a la crítica pero a la conveniencia

con la mesura que se supone a los dirigentes políticos a la hora de valorarlas por el obligado respeto institucional que debe presidir las relaciones entre los poderes públicos esto lo tuvo que recordar en varias ocasiones el consejo general del poder judicial recientemente también hemos visto las declaraciones del señor ibarra presidente del tribunal superior de justicia del país vasco respaldando la actuación

de instrucción que ha instruido la causa del caso de miguel por eso queremos preguntarle lehendakari con todo este cúmulo de descalificaciones que intentan desprestigiar y presionar la actuación de la justicia cuando las resoluciones no son de su agrado no les gustan les perjudican no les

queremos preguntarle si es propósito del gobierno vasco seguir desprestigiando y presionando la acción de la justicia cuando los procedimientos y resoluciones judiciales
no son de su agrado eskerrik asko garrido andrea

carecen de una justificación mínimamente razonable y son un exceso no justificado de crítica a las decisiones judiciales

kontrol saio batean esan zuen insisto en lo que es el respeto al auto del juez y al procedimiento judicial y en el momento

y dicte sentencia si el gobierno vasco en nombre del cual hablo se viera afectado le garantizo que volveremos a actuar con la máxima rapidez

el lehendakari pero me ha respondido usted más que nada porque también el lehendakari ha hecho declaraciones en relación

desde luego impropias de un lehendakari y desde luego que no se corresponden con la debida cortesía y respeto institucional al resto de poderes

del estado resto de poderes públicos en este caso al poder judicial y he hecho un repaso con algunas declaraciones en concreto usted claramente se ha querido

porque todas estas declaraciones todo este cúmulo y elenco de declaraciones ponen de manifiesto una forma de actuar del partido nacionalista vasco el partido nacionalista vasco cuando hay resoluciones judiciales sentencias

o porque van en contra de sus intereses o porque como decía

dejan en evidencia esa imagen inmaculada que ustedes nos han querido trasladas

desprestigiar la labor de los jueces con declaraciones muy claras dirigidas a arremeter contra los jueces o no es arremeter contra

el trabajo que ha hecho pero lo que no se puede decir de un juez es que ha copiado el ochenta por ciento de las conclusiones de investigación del parlamento vasco y que ha hecho un corta y pega pero quién es el señor egibar para meterse con un juez que ha sacado una oposición que está en un juzgado que ha

demasiado al señor egibar pero es que el caso ha sido bastante sangrante

desprecio en esas declaraciones muy claras que buscaban

judicial cómo me puede decir que esas declaraciones entran dentro porque usted ha venido a decir aquí que entran dentro casi de la crítica normal que se puede ser a la actuación de un juez hombre no

a poner un poco las cosas en su sitio y un poco a resaltar la labor de instrucción realizado por un juez claro que se puede criticar todos podemos criticar determinadas cosas pero

el consejo general del poder judicial en reiteradas ocasiones desde la mesura

que desde luego debe acompañar al debido respeto institucional entre los poderes públicos y aquí reiteradamente y este gobierno también y por eso lo hemos formulado esta interpelación al lehendakari

claramente y no ha respetado a otras instituciones

en sus resoluciones judiciales cuando ustedes esas resoluciones judiciales no les gustan ustedes las critican y pasando la raya que usted decía

institucional claramente por eso lo hemos preguntado si ustedes van seguir en esa tesitura porque imagino que pronunciamientos judiciales seguirá habiendo que

pero nos aguantamos pero parece que el partido nacionalista vasco

pronunciamientos judiciales en una dirección cuando no le gustan salta y arremete claramente contra el poder judicial y contra sus resoluciones por eso es importante

de crítica constante pero crítica constante que intenta desprestigiar la actuación de la justicia cuando se dictan resoluciones judiciales que a ustedes no les gustan que no son de su agrado que les

y tratan de esclarecer hechos que parece que ustedes en el fondo no quieren que se esclarezcan

señora garrido usted ha vuelto a intentar reproducir frases críticas

jueces y tribunales concretos

pero claro no ha traído a colación una sola cita de salida de este gobierno

y me está hablando de lo que ha dicho un líder político un parlamentario de esta cámara que tiene tanto derecho como usted para expresarse públicamente me trae a colación expresiones que han hecho insisto en gobiernos anteriores en otros ejecutivos líderes que no son ni del partido nacionalista vasco que pertenecieron a gobiernos de coalición como hace usted con el señor azkarraga que ha citado que no sé a qué colación

criticar la labor de este gobierno asique este gobierno en relación

no ha ejercido un derecho a la crítica de las resoluciones judiciales más allá de lo que está permitido y es lícito y la prueba más elocuente hay un indicador que en este sentido que es

y es la reacción de los propios jueces afectados cuando los jueces no consideran que tiene que solicitar el amparo del consejo general del poder judicial

que las críticas que se han dirigido a sus resoluciones no superan el límite de lo tolerable y aquí no ha habido hasta la fecha que yo sepa ninguna dirigida a este gobierno

de muchos magistrados y de muy relevantes nada menos que trece de dieciocho de la sala penal del tribunal supremo que han ido contra declaraciones hechas por eminentes miembros

del gobierno central del partido popular que venga usted aquí a reprochar a este gobierno lo que no puede reprochar a este gobierno porque para alimentar su argumento tiene que echar mano de declaraciones hechas por gente que no forma parte de este gobierno

derechos legítimos y que sea precisamente usted cuando este asunto ha sido recientemente llevado al consejo general del poder judicial precisamente en relación con declaraciones hechas y muy duras

si eso lo hubiera hecho una autoridad político administrativa refiriéndose a una resolución judicial en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación al diario de la razón

no lo he dicho nadie de este gobierno ha dicho nada semejante parecido ni de lejos a esto que dijo el ministro de interior y que provocó inmediatamente la reacción de trece de los dieciocho magistrados de la sala de lo penal del tribunal supremo

para reprocharnos el haber actuado ejerciendo crítica a las resoluciones judiciales que no vamos a renunciar a hacerlo cuando consideramos que haya que hacerlo por supuesto que yo he dicho que no no no yo he dicho que es legitima

siempre que la crítica no entraña acusación no entrañe denuncia

las resoluciones judiciales como las resoluciones de este parlamento y las de cualquier otro poder público son susceptibles de crítica no me dirán que el único poder público cuyas resoluciones no pueden ser objeto de crítica

las de los jueces y tribunales no me digan que

usted hace referencia también a unas palabras del presidente del tribunal superior de justicia del país vasco

que a él no le gustan que no comparte las cosas que se han dicho cree que son excesivas pero que les acoge la libertad de expresión ha dicho la libertad de expresión da acogida a esas y a otras más barbaridades eso es lo que ha dicho pero no ha negado que

que le parece desmesuradas pero que están acogidas a la libertad de expresión

más que para hablar en nombre del gobierno en relación con lo que el gobierno ha hecho y el gobierno no ha hecho una sola declaración que haya superado en relación con la crítica que

que haya superado los límites que creo yo que son insuperables que incurren en la descalificación

y eso es lo que yo reafirmo en este momento y por supuesto que el lehendakari no lo ha hecho porque

en esta misma tribuna hizo una declaración básica y fundamental de respeto

gracias señora presidenta señor lehendakari hace dieciséis meses

y recalco suyo porque lo aprobaron sin aceptar ninguna sugerencia de los grupos de la oposición por lo tanto sin acuerdo con ninguno de los grupos parlamentarios salvo el partido nacionalista vasco con el rechazo de las asociaciones de víctimas del terrorismo y también con el rechazo del gobierno de españa su gobierno en vez de

memoria y convivencia optó por lo contrario y eso a nuestro juicio

un mal comienzo que además auguraba el fracaso de su plan lehendakari nosotros pensamos que después de estos dieciséis meses más allá de desarrollar programas con nombres solemnes más allá de contratar informes a tutiplén

de su gobierno en esta materia es decepcionante y sin embargo contra toda evidencia su secretario de paz y convivencia en muchas ocasiones y usted recientemente

por eso le preguntamos cuáles son las razones que le llevan a realizar

a pesar de las evidencias sobre los objetivos obtenidos del plan de paz y convivencia eskerrik asko ares jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor ares el acuerdo de consejo del gobierno que tras encargo por parte de esta cámara aprobó el plan de paz y convivencia y que sobre las aportaciones de los miembros

no cuenta con el beneplácito de otros grupos parlamentarios este plan más que el del grupo parlamentario que sustenta al gobierno vasco podríamos hablar mucho también de las cosas que se dicen en reuniones y de lo que al final luego se hace pero en todo caso el propio acuerdo de consejo del gobierno reguló el sistema para su seguimiento y evaluación

dos informes de seguimiento semestral que han sido remitidos a este parlamento han puesto de manifiesto que las dieciocho iniciativas comprometidas en el plan está en marcha con un grado satisfactorio de cumplimiento de las previsiones establecidas y esta es una realidad objetiva no es que lo diga yo ni que lo diga el secretario general de paz y convivencia

porque hemos cumplido lo comprometido hemos realizado los informes de clarificación

nuestras iniciativas en las políticas públicas de reconocimiento y reparación

el mapa de la memoria o la iniciativa retratos municipales de la vulneración del derecho a la vida hemos firmado el convenio con las universidades vascas

para los derechos humanos hemos puesto en marcha el programa elkarrekin de cultura de convivencia

el convenio con e i te be y con el consejo de la juventud le invito señor ares a que trascendamos del microclima político y analice la incidencia real de este plan que reflejan precisamente los estudios de la universidad de deusto de la universidad del país vasco

yo creo que es constatable que el clima social es de satisfacción y que por lo tanto la valoración es positiva eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna ares jauna zurea da hitza

porque no se puede confundir hiperactividad o elaboración de informes con resultados porque un simple análisis

fijados en su plan pone de manifiesto que esta ha fracasado si no veamos en primer lugar el plan decía que tenía como objetivo contribuir al desarme

se ha avanzado en algo no y lo que es peor

el segundo gran objetivo de su plan era conseguir los micro acuerdos

porque algunos no vamos a estar dispuestos a rebajar principios éticos y democráticos para alcanzar estos acuerdos no vamos a trabajar para diluir responsabilidades o facilitar que se diluyan responsabilidades o que se puedan las responsabilidades de quienes apoyaron y justificaron el terrorismo en materia de memoria lehendakari estamos peor

dos años hay menos consenso que hace dos años y las víctimas están más alejadas de su gobierno y lo están

su plan de paz y convivencia no es tal porque no recoge

amenaza a secuestros a extorsión tampoco ha habido ningún avance en política penitenciaria no la ha habido ustedes no han convencido

ni han convencido a los presos de eta y yo por eso le pido que haga autocrítica le pido que asuma que su plan no es útil para avanzar y le emplazo a que podamos transitar por el diálogo para recomponer los acuerdos

para juntos reclamarle a eta que se disuelva definitivamente para juntos trabajar en una memoria y un relato veraz de lo ocurrido en este país

y reconocer que nunca hubo ni habrá justificación para practicar actividades terroristas para juntos

no un brindis al sol como están planteando ustedes para juntos en definitiva lehendakari

decente y sustentar la convivencia en valores éticos y democráticos como los que hemos acordado eskerrik asko ares jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor ares me entristece realmente escuchar nuevamente estas argumentaciones por boca de usted me entristece porque reflejan que ni siquiera se paran ustedes a leer detenidamente lo que el texto del plan de paz y le cito otra vez los cinco

los cinco compromisos que planteábamos a todos los grupos de la cámara en ese plan de paz y convivencia

resolución del conflicto cinco compromisos que le invito a que lea si no se corresponden con todas las demandas que usted ha hecho señor ares mire

interpelar al lehendakari o preguntar al lehendakari solamente por una cuestión y es por hacer referencia a las palabras del señor salaburu

de asesinato extorsión o secuestro que no se contemplan en el plan de paz y convivencia mire se critica el plan porque no incluye las palabras asesinato extorsión o secuestro estuve de la fundación fernando buesa escuché al señor salaburu y me pareció absolutamente injusto injusto y lo digo así y es cierto pero es cierto

las incluyen el suelo ético que ustedes aprobaron con el partido nacionalista vasco y con aralar en la legislatura pasada es cierto porque tampoco incluyen esas palabras

del que usted era miembro es cierto que lo firmó el gobierno lópez con los agentes educativos y no contemplan estos términos y tampoco el plan de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia de la anterior legislatura

es cierto que yo he hecho mención a esas palabras en el reconocimiento injusto del daño causado y en la lectura crítica del pasado en el acto de

lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta señora consejera

en sesión celebrada el catorce de febrero de dos mil trece hace veintidós meses exactamente se aprobó en esta cámara

no de ley en la que se le instaba al gobierno principalmente a dos cosas primero elaborar en el plazo más urgente posible el reglamente que desarrolle la gestión del fondo de catástrofes

un inventario de daños por cada episodio de inundación

además decíamos que instábamos a promover un acuerdo entre la administraciones competentes propietarios usuarios y representantes del sector primario de las zonas del entorno del zadorra ríos del sur

con el objeto de programar de manera urgente el conjunto de medidas necesarias para de manera eficaz dar

en el territorio histórico de álava siempre enmarcadas en el cumplimiento de la legislación vigente señora consejera queremos saber el grado de cumplimiento de esta iniciativa aprobada en esta cámara

eskerrik asko presidente andrea señora lópez de ocariz como bien dice usted el catorce de febrero de dos mil trece se aprobó en esta cámara una proposición no de ley y

en la comisión de política agraria y alimentaria celebrada el doce de noviembre de dos mil catorce el gobierno presentó un borrador de

para daños de naturaleza catastrófica o daños derivados de fenómenos climáticos en los ámbitos de agricultura ganadería silvicultura e infraestructuras rurales

presentaran comentarios y sugerencias y no se ha recibido ninguna a este documento respecto a la elaboración del inventario de daños por episodios de inundación

se recibió en el departamento el documento elaborado por la diputación foral de álava sobre los daños en diversas zonas del territorio histórico este departamento evidentemente aceptó el informe como tal puesto que es la administración más cercana y la que realmente tiene competencias y sabe de lo que está hablando

el consejo de diputados de la diputación foral de álava en sesión de veintinueve de enero de dos mil trece adoptó un acuerdo solicitando la declaración de zona catastrófica a una serie de ámbitos que eran municipios de arroz iruña de oca vitoria gasteiz el burgo zalduondo y diversos municipios de montaña alavesa y valles alaveses

de cultivo así como daños significativos en caminos rurales y otras infraestructuras agrarias

el ochenta y tres por ciento de superficie de cultivos extensivos está asegurada y estos son los cultivos que básicamente estaban afectados

para poder ser beneficiario del fondo de catástrofes el riesgo no debe estar incluido

inicial de estos daños se considera que no debe ser

lo referido a daños en infraestructuras agrarias fue valorado aproximadamente en un millón setecientos mil euros por tanto se decidió

a la financiación de la reparación de caminos rurales recordaran que el año dos mil trece el presupuesto estaba prorrogado

y por tanto el gobierno vasco publicó el trece de diciembre de dos mil trece una resolución

de la reparación de caminos rurales de este territorio y se dieron una

de ayudas de al rededor de tres millónes de euros esta es la situación en lo que se refiere al fondo de catástrofes y su gestión eskerrik asko tapia andrea

la realidad es que a día de hoy abril dos mil quince

no se cumple el capítulo sexto de la ley de política agraria y alimentaria artículos ochenta y tres y ochenta y cuatro que se demuestra claramente la voluntad

del consejero del grupo nacionalista en el dos mil ocho a iniciativa propia

y por lo tanto necesario que esa ley contemple un capítulo específico de daños catastróficos

y la creación de un fondo de catástrofes y los requisitos mínimos para ser beneficiario del mismo y a día de hoy eso no está regulado

se compromete a cumplir la ley o no o vamos a seguir sin cumplir la ley como le decía sigue sin regularse esta ley por lo tanto está incumpliendo la ley porque los presupuestos de este ejercicio ya no contemplan en el dos mil quince ya no contemplan la partida de fondo de catástrofes ya no lo contemplan han inventado una partida

qué es gestión de riesgos que entiende el gobierno y su departamento por gestión de riesgos no sabemos a qué responde por lo tanto está incumpliendo la ley porque la ley dice que los presupuestos tendrán una

y en dos mil quince no existe esa partida y además es que sigue sin regularse por lo tanto señora consejera creo que tiene unos deberes pendientes que los tiene que hacer

yo creo que me gustaría saber cuál es el criterio que tiene usted para el pleno desarrollo de esta ley y si realmente es voluntad de su gobierno desarrollarla lo que conocemos hasta el día de hoy y lo que nos han presentado y forma en gran medida parte del trabajo del gobierno anterior está claro que su capacidad de gestión es ampliamente mejorable está demostrado que el pnv sabía gestionar

abundancia económica y amplia red clientelar cuando esos dos parámetros son débiles se les ha olvidado gestionar está claro y demostrado

su voluntad cumplir la ley desarrollar esta ley nada más muchas gracias eskerrik asko ocariz andrea

eskerrik asko presidenta andrea señora lópez de ocariz a esto último ni voy a entrar de verdad es que no merece la pena

desde luego en la preparación del decreto luego en el decreto correspondiente de zonas catastróficas debe estar regulado entiendo yo lo que se considera por tanto no me haga repetirle ciertas cosas que ya le he dicho en la primera intervención en segundo lugar hemos trabajado además con una guía de buenas prácticas de mantenimiento

lo de zona catastrófica como tal sabe usted perfectamente que no existe y que no se encuentra bien definido en ninguna ley luego a esa calificaciónno es adecuada y es la de gestión de riesgos la que aparece por eso está dentro del presupuesto de esa forma

es que en la última inundación existe un decreto de gobierno para hacer frente al mismo por tanto señora

ocariz no me venga con que no hacemos las cosas que hay que hacer porque realmente se observa que sí es cierto eskerrik asko tapia

itxaso jauna zurea da hitza señora presidenta buenos días señor consejero

pasado veintiséis de marzo los grupos parlamentarios presentes en esta cámara acordaron dar curso a una iniciativa de este grupo parlamentario el grupo socialista por el cual se instaba al gobierno a realizar una campaña para facilitar la ocupación de locales vacios existentes en la promociones públicas y apoyarlo en un programa para la implantación de negocios y el fomento de la creación de empleo para la pymes

básicamente es cuándo tienen previsto adoptar las medidas que se aprobaron en aquel acuerdo parlamentario eskerrik asko

antes incluso de que parlamento adoptara el acuerdo al que usted ha hecho mención

desde la viceconsejería de vivienda y a través de visesa ya había empezado a explorar esa posibilidad de poner todos sus recursos a facilitar no solo el acceso a la vivienda que es su objetivo esencial

porque las políticas de vivienda cumplen dos objetivos por un lado sustancial que son las políticas sociales y por otro segundo generador de actividad económica y de empleo

hace seis meses exactamente el veintiuno de octubre de dos mil catorce en el consejo de administración de visesa se presentaron diferentes propuestas

el alquiler con incentivos la transformación de local a vivienda en este caso en las capitales de los territorios históricos que cuenten con normativa municipal para ello y una bolsa de locales para entidades con fines de inserción social

del dieciséis de marzo al treinta y uno de marzo se inició una campaña de comunicación

de las oficinas de visesa y también en los medios de comunicación en las que se informa sobre los locales comerciales que se ofrecen en alquiler y también sobre

con importantes incentivos para fomentar el emprendimiento entre las personas que opten por poner en marcha una actividad empresarial incluida el autoempleo

ya anticipó efectivamente que el gobierno llevaba trabajando en esta dirección desde hacía meses

la razón de las preguntas que formulamos desde nuestro grupo lo que pretende es conocer el grado de materialización real de los acuerdos porque si bien es verdad que llevan trabajando desde hace meses todo ese parque de locales de bajos comerciales desocupados

cuándo estarán destinados al fin para el cual se adoptó aquel acuerdo porque claro si llevan tanto tiempo trabajando lo razonable sería

esas acciones de gobierno esos trabajos y ese parque de locales vacíos estuvieran ya destinados a esas actividades de emprendimiento a esas actividades económicas y por eso nuestra insistencia porque

de la retórica y de las explicaciones siempre

lo que queremos es ver materialización concreta realización es decir si

y daban un número de ciento doce pero gracias al acuerdo que adoptamos con el grupo nacionalista se ampliaba a todos los locales porque hablábamos de los que llevaran

ese stock de locales vacíos van a estar efectivamente destinados a estos menesteres a estas actividades

la cuestión nuclear porque yo entiendo que efectivamente trabajo se hace de todo tipo pero

los resultados las explicaciones vienen bien son atendibles nos las creemos pero queremos ver esa materialización esa concreción

de esta pregunta es decir para cuándo estima usted señor consejero que ese acuerdo se terminará de concretar en una realidad y esos locales quedarán definitivamente vacíos ocupados por actividades de emprendimiento y de actividad económica

eskerrik asko voy a empezar diciéndole señor itxaso que cuando el departamento y visesa

la ubicación de los edificios en los que realizamos esas viviendas no se toma la decisión en función de la idoneidad

salen naturalmente de la construcción de las viviendas resulten los lugares idóneos para que sean ocupados como locales comerciales y por lo tanto se utilizan criterios residenciales y por lo tanto efectivamente

dicho lo cual en este momento desde visesa tenemos una oferta de ciento veintiuno locales en alquiler o en alquiler con opción de compra en los tres territorios y con buenas condiciones otra cosa es que los que vengan

en el pago de la renta por hacer obras de reforma un veinticinco por ciento durante seis meses por cada puesto de trabajo que generen con un máximo del cincuenta por ciento de bonificación y además tenemos otros ciento quince que son propiedad del departamento de empleo

y nuestra intención es aplicar aquí las mismas condiciones a todos los locales del gobierno nosotros lo que podemos hacer es

evidentemente que después se dirijan a nosotros a pedírnoslos depende de otros factores que a veces escapan de nuestras propias posibilidades y le he dicho que el primero de ellos es la no idoneidad de muchos de ellos para ser utilizados como locales comerciales que después aporten rentabilidad a los que

tanto formales como constructivos tipológicos urbanísticos y significativos como para formar parte del patrimonio cultural vasco con la categoría de monumento hori batetik

las administraciones públicas deben garantizar la conservación de un bien cultural de tan alta significación para el patrimonio cultural regional y nacional no resultando admisible en nuestra opinión

si no siquiera cualquier alteración de su estructura espacio y valores formales internos que menoscabe su unidad arquitectónica y conceptual beraz jaurlaritzari dagokio zer eta nola

azterketa ekonomiko bat ere egin da eraikinaren finkatzea eta eraberritzea baloratzeko como consecuencia de estos pasos previos y atendiendo a las recomendaciones la mejor alternativa es la protección del edificio mediante su inclusión en el inventario general del patrimonio cultural vasco de modo que se pueda compatibilizar la conservación y el uso como mejor fórmula para garantizar el futuro del edificio eta

en cuanto al compromiso económico el gobierno vasco con el edificio bellas artes en el presupuesto del dos mil quince

para la elaboración del proyecto de consolidación y restauración del edificio eskerrik asko uriarte andrea breñas andrea zurea da hitza

bien cultural inventariado y no calificado legebiltzar honetan erabaki zen bezala orduan ez duzue errespetatuko

kontuan hartu dira en primer lugar el estado de conservación del palacio bellas artes no es de ruina arquitectónica aunque presenta algunos problemas derivados de filtraciones de agua en segundo lugar los trabajos necesarios para la consolidación del edificio se cuantifican entorno a setecientos mil u ochocientos mil euros y no dos millónes como se afirmaba

y en tercer lugar algo que resulta primordial es que para la correcta conservación del edificio resulta necesario que se garantice una reutilización compatible con el edificio protegido

admitiendo cualquier tipo de uso terciario público de equipamiento o residencial y permitiendo la apertura de nuevos huecos de la fachada exterior siempre que sean necesarios para los usos previstos y sean autorizados por la diputación foral de gipuzkoa y el consejo asesor de patrimonio arquitectónico monumental de euskadi hau da emandako babes maila egokia da

desde mil novecientos ochenta y cinco tenemos en esta comunidad competencia en becas y ayudas al estudio

la única comunidad autónoma que las tiene podemos marcar características requisitos cantidades etcétera las becas de colaboración las hemos venido convocando

y desde luego han sido muy esperadas y muy bien valoradas por la comunidad y sobre todo por el alumnado universitario

y van destinadas precisamente a incorporarlos ha conectarlos con el mundo del empleo en los centros docentes y sobre todo en grupos de investigación en actividades

dónde están esas becas de colaboración este año cuándo las va a convocar eskerrik asko celaá andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

beste zeregin hutsalago batzuetara jartzen baitzen ikaslea por tanto este programa necesitaba de una revisión

sin embargo dichos cambios seguían sin ser suficientes al efecto de mejorar el objetivo de sensibilizar al alumnado y fomentar las vocaciones investigadoras

las universidades del sistema universitario vasco están ahora en el diseño de una convocatoria diferente que permita fomentar la vocación investigadora con los incentivos y resultados adecuados

el objetivo es poner en marchar una convocatoria piloto este mismo año

en la que se involucre más directamente a los grupos de investigación el eje principal debe ser la garantía de que el alumnado sea introducido a la investigación

se analizarán los resultados para implementar una convocatoria definitiva

que cumpla el cometido de generar interés y despertar vocaciones investigadoras entre el alumnado eskerrik asko uriarte andrea celaá andrea

no puedo estar de acuerdo en esa valoración que usted hace de que las becas de colaboración no funcionaban bien si no funcionaban bien lo que procede es introducir los cambios necesarios tal y como se hizo desde el anterior gobierno usted dice que están en el plan universitario pero hete aquí que las buscamos y las buscamos y no las encontramos en el plan universitario ni las encontramos nosotros ni las encuentra las universidades

en qué lugar están las becas de colaboración las becas de colaboración usted las heredó en dos mil doce con una consignación presupuestaria de

usted lo redujo en dos mil trece en su convocatoria de dos mil trece a pesar de ser una prórroga presupuestaria

el dos mil catorce volvió a sacarla con medio millón de euros y el dos mil quince no aparece usted señora

no tiene un buen capítulo de becas se retrasan las becas no sé si se ha fijado que en las becas generales incluso este presupuesto de dos mil quince no ha contemplado las becas del curso dos mil quince dos mil dieciséis un error importante una equivocación importante con usted han desaparecido las becas de excelencia

han desaparecido solo se llaman becas de excelencia anudadas a las becas generales

con usted han desaparecido las becas de idiomas en un mundo globalizado que necesitan las lenguas extranjeras como herramienta singular y con usted señora

cómo va a contribuir desde su sector a ese plan de empleo que dice quiere estimular este gobierno desde la función pública con qué con qué las becas predoctorales que son contratos se han reducido en casi una cuantía de un treinta por ciento lehen aukera según palabras del propio representante del gobierno del propio portavoz no han dado no está dando los resultados apetecidos su ope señora se ha quedado en doscientos cuarenta plazas cuando precisaban mil dígame usted señora

sin becas de colaboración que también incorporan al mundo del empleo a la actividad de la investigación dígame usted señora cómo desde
va a contribuir usted al fomento del empleo eskerrik asko celaá andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

empezando casi por el final señora celaá pudiendo estar de acuerdo con

distintos puntos con usted no estoy de acuerdo en que las becas de colaboración fomentaran y ayudaran a fomentar o la inserción laboral del alumnado

porque al alumno se le da por expediente no por necesidades económicas

departamentos servicios etcétera de la universidad que podrían estar

y total no servían simplemente lo que era su vocación era fomentar esa vocación investigadora es decir conseguir que el alumno le preocupe le guste investigar saber y realmente pues ese es el objetivo

las becas de colaboración que teniendo ese objetivo no cumplían ese objetivo y es por ello que de acuerdo con las universidades lo que estamos intentando analizar dentro del plan universitario y lo que se va a implementar es un programa piloto de ayudas para el fomento de la vocación investigadora en el alumnado de grado y máster y es en ello lo que estamos trabajando nosotros lo que estamos intentando fomentar estas vocaciones esta vocación esta formación en la propia investigación porque eso sí posteriormente una vez que los alumnos empiecen a trabajar en los grupos de investigación se formen en el ámbito de investigación puedan dar el salto a lo que es el tejido empresarial

generar empleo a nosotros nos importa también los alumnos es decir que los alumnos tengan estas ayudas para realmente llegar hasta ese punto pero también desde esa misma forma que nos importa lo que es integrar al propio alumno y darle esa formación también prioridad para el gobierno el rigor en la gestión y la asignación de los fondos públicos

hartu beharrekoak son fundamentalmente dos los aspectos a tener en cuenta

y la salud la composición de la dieta y como usted muy bien ha señalado la seguridad de los alimentos

consumir frutas y verduras frescas reducir la ingesta de grasas saturadas y de carnes rojas

y reducir el consumo de alcohol tienen comprobada su relación con una mayor y mejor

es decir tenemos capacidad cada uno de nosotros para tomar medidas que mejoren nuestra salud si cuidamos nuestros hábitos y entre ellos la alimentación

ezinbestekoa dugu osasuntsu egoteko ondo janez gero luzaroan izango dugu osasuna en lo que a la seguridad de los alimentos y a la contaminación biológica y química se refiere

que ambos factores estén controlados en este sentido puedo asegurarle que desde la dirección de salud pública y adicciones se trabaja los técnicos de la dirección realizan habitualmente

de ambos tipos de contaminación se vigilan estrechamente los residuos y los contaminantes químicos en los alimentos tanto animales como vegetales y cuando se detectan

se toman medidas desde el departamento de salud defendemos una alimentación saludable en línea con la recomendación de reducir al máximo los aditivos y otros productos químicos

creemos que la alimentación ecológica es saludable

se da por cierto que son alimentos que carecen de productos químicos añadidos pero también es cierto que el resto de alimentos hoy en el mercado entendemos que tienen garantías de seguridad

nos parece correcto el consumo de productos ecológicos es obvio que en el ejemplo que usted ha puesto de un pollo que pique el suelo y corra pues probablemente es más nutritivo incluso pueda tener un mejor sabor lo cual no quiere decir que el resto de alimentos que salgan al mercado hoy en día

garantizados para la seguridad de la salud desde el gobierno vasco impulsamos la alimentación saludable impulsamos acciones para promover buenos hábitos alimenticios en la población y también

como usted conoce y figura en el plan de salud estamos trabajando en una estrategia

el sector productor el sector de la transformación la vigilancia de la calidad y seguridad de los alimentos la vigilancia de los patrones de consumo alimentarios

y también la formación de la misma para la elaboración y el desarrollo de la estrategia que ahora mismo estamos trabajando

del sector agrícola vamos a contar con la industria de transformación

vamos a contar también con representantes de la educación los comedores escolares nos parecen muy importantes y la universidad y también entendemos que los medios de comunicación

y una buena herramienta la traeremos al parlamento junto con el resto de medidas puestas en marcha a raíz del plan de salud dos mil trece dos mil veinte

sufría unas graves inundaciones sin duda las más graves de los últimos años pero esta situación

ya que este municipio aunque no con tanta intensidad ha sufrido las crecidas del cadagua en numerosas ocasiones esta vez las fuertes lluvias junto con las obras hidráulicas pendientes de ejecución por gran tiempo provocaron una anegación en el municipio de considerables dimensiones que según el consorcio de compensación de seguros asciende a tres millónes de euros

así como instalaciones municipales construidas con el esfuerzo de todos los vecinos como el campo de fútbol la reciente acabada cancha polideportiva o la planta baja de un colegio quedaron destrozados por el agua

como dice la pregunta la primera obra para aliviar la situación del municipio y prevenir las inundaciones era ejecutar el proyecto de mimetiz que limitaría el riesgo para dos mil seiscientos vecinos

el mes de marzo estaba previsto la aprobación inicial aunque hemos conocido que se acaba de aprobar muy recientemente el proyecto

y ya después de la aprobación de este proyecto se estaría en disposición de sacar a concurso las obras para la ejecución del mismo lo que ocurre es que ese extremo no está tan claro

alrededor de seis millónes y medio de euros que consideramos que es imprescindible ejecutar cuanto antes pero para ello lo que debiera de existir es una partida

no sabemos si existe en este presupuesto o si es necesario esperar al dos mil dieciséis para que las obras se materialicen y la angustia que los vecinos de zalla viven cada vez que llueve se pueda cesar y lo mismo ocurre con el barrio de aranguren el más castigado sin duda por las

por ello la pregunta es clara queremos saber cuáles son los planes a corto y medio plazo por parte de su gobierno
para tratar las infraestructuras hidráulicas en los dos barrios y tratar de prevenir con ello las inundaciones en el municipio de zalla eskerrik asko llanos andrea erantzuteko

bai eskerrik asko mahaiburu andrea efectivamente como usted bien ha

una resolución del director general de ura por el que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el proyecto de defensa contra inundaciones del río cadagua a su paso por mimetiz en el término de zalla

hay una serie de soluciones hidráulicas contempladas en ese proyecto por un lado la sustitución del puente del charco por otro de mayor sección hidráulica

por otro lado se va a crear una corta seca o canal de derivación entre instalaciones deportivas y el sector de arechaga con el fin de que funcione como un segundo cauce en episodio de aguas altas esta vaguada en cuyo fondo discurrirá el arroyo sollano generará un espacio verde de ocio en aguas de abajo

además se ha incluido en el proyecto un nuevo puente sobre la corta de arechaga

acondicionando una vaguada fundamentalmente en la margen izquierda como usted bien ha resaltado está expuesto al público

bastante inmediata podremos estar ante la aprobación definitiva de este proyecto y a partir de ahí consignar los créditos necesarios

ponerlo en marcha lo antes posible pero también hay una cuestión previa

que es lo que debe hacer el ayuntamiento el ayuntamiento nos pondrá a disposición los terrenos y nosotros haremos todo lo posible por licitarla cuanto antes esta obra que entendemos absolutamente prioritaria en cuanto a la zona de aranguren

de manera que se reduzca el riesgo de inundabilidad se estudiará exhaustivamente el efecto de los diferentes obstáculos y las necesidades de sustitución o demolición de estos

los dos puentes de feve el puente de acceso a la papelera de aranguren

pasará seguramente por la eliminación o sustitución de los obstáculos que existen además del aumento de la capacidad hidráulica en algunos tramos del cauce
pero estamos todavía en fase de definición de estos trabajos eskerrik asko

gracias señora presidenta bien señora consejera la verdad es que zalla junto con el resto de los encartaciones es una zona que se siente olvidada por el gobierno

nacionalista vasco y además se siente maltratada y en desigualdad de condiciones con relación a otros

que no coincide con el color de su gobierno no sea un obstáculo para que de verdad se cumpla lo que se ha dicho en muchas ocasiones que es una prioridad porque cuando se hablaba de las obras

a que la eliminación de la inundabilidad en esta zona iba a ser una prioridad y sin embargo hoy usted aquí no ha dado plazos ni se ha comprometido

es de la concesión de esta presa está a punto de concluir pero tampoco a dicho nada

las alegaciones van a ser rápidas la cuestión está en que haya primero consignación presupuestaria que no sabemos porque no nos ha dicho si la hay en este presupuesto y si la va haber para el siguiente

de conseguir que las obras se prioricen y que las obras comiencen cuanto antes y usted tampoco hoy aquí ha dicho nada de esa voluntad política ha dicho que se hará en cuanto se pueda

pero la cuestión ya le digo es dinero consignación presupuestaria y voluntad política y creo que es una obligación de este gobierno

sino acordarse ahora priorizar ahora y ejecutar las obras ahora porque creo

varios planos con los puntos negros de la comunidad autónoma los puntos negros en materia de inundaciones

sobre nuestro territorio se plantean las actuaciones también teniendo en cuenta nuestras disponibilidades presupuestarias

tiene puntos negros no tiene puntos de colores no tiene puntos verdes rojos azules no son negros todos

y actuamos en función de la priorización que nos marcan las diferentes planificaciones y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria claro

de la capacidad inversora de ura se destina a la prevención de inundaciones y a la corrección de esos puntos negros este es uno

y hace falta no solamente consignar presupuestariamente hacen falta también los terrenos las dos cosas yo sé que el ayuntamiento está aplicado en ello y que va a estar y que las alegaciones efectivamente como usted dice seguramente se van a resolver de una manera fácil espero que así sea confío en que así sea

en la consignación de los créditos necesarios y entre todos
iremos resolviendo los problemas esa es la cuestión eskerrik asko